todo ello derivado en situaciones más o menos complicadas lo que no ha concluido a pesar de los lógicos descensos recaudatorios en que el gobierno vasco no haya seguido atendiendo puntualmente todos sus compromisos sociales además de todo sabemos de las planificaciones y de los esfuerzos que el gobierno vasco está dedicando a dificultar el avance de la crisis y a restaurar el tejido

que ha sido es y será nuestro modo de crecer y de estructurar la sociedad

un alegrarnos conjuntamente por quienes van abandonando el desempleo y ven el futuro con más esperanza

una idea de que aunque seguramente queda mucho por hacer se va acabando aquello de que solo nos íbamos a levantar con malas noticias

que tubos reunidos ha decidido levantar en euskadi y más concretamente en araba recientemente la empresa tubos reunidos ha anunciado la creación de una

junto con la empresa japonesa mite para la puesta en marcha de una nueva inversión de especial importancia

independientemente del optimismo que traslada tal noticia y que todos somos conscientes de que la senda de la recuperación se construye con la regeneración

en que con motivo de este anuncio se ha mencionado desde diferentes ámbitos que la atracción de esta inversión ha sido posible gracias a la colaboración público privada

qué valoración hace del anuncio hecho por tubos reunidos y qué papel han jugado las instituciones y más concretamente el gobierno vasco

oso gaitasun teknologiko handia dutelako se trata de una inversión de treinta millónes de euros y ochenta puestos de trabajo en una primera fase que pueden llegar hasta doscientos

en alza y que desde luego tiene un gran futuro en una primera fase trabajando con la diputación foral de álava y también de forma interdepartamental en el propio gobierno se van a poner en marcha

decíamos en subillabide en una zona cercana a la planta de amurrio que tiene tubos reunidos ahora y cercana también al puerto de bilbao

a toda esta operación y hemos estado al tanto y hemos sido conscientes hemos trabajado de la mano con la propia empresa insisto dentro del gobierno y con la diputación foral de álava

qué instrumentos hemos puesto a disposición entre todos de esta empresa por una parte todos los instrumentos financieros de los que dispone el gobierno tanto en lo que se refiere a ampliaciones de capital posibles como en distintos prestamos y en definitiva vías de financiación en condiciones

pero en condiciones también favorables y bien estructuradas en segundo lugar a través de araba agencia de desarrollo se ha trabajado con la diputación foral de gipuzkoa para poner a disposición de esta empresa lo que va a ser el suelo y la nave sobre la que se va a desarrollar el trabajo a todo esto se ha acompañado con otros instrumentos de los que dispone el gobierno como son

otros dos instrumentos que me gustaría resaltar que son el sistema de formación profesional vasco y los servicios de lanbide servicios de lanbide en cuanto que se va a trabajar con la empresa buscando y definiendo los perfiles que van a ser necesarios dedicados sobre todo a fabricación mecánica y a mecatrónica industrial

ubicados en vitoria para desarrollar esta formación trabajando además los requerimientos específicos los conocimientos que se necesitan para poder acceder a esos puestos de trabajo en caso de que fuera necesario el poder trabajar también en la propia empresa en japón durante un mes lanbide pondrá a disposición todos aquellos instrumentos de los que dispone en este momento por tanto estamos ante una operación industrial que aporta actividad valor tecnológico y

opciones de suelo que tenemos y desde luego una oportunidad importante para potenciales proveedores de esta empresa tanto en máquina herramienta como otro tipo de servicios auxiliares y que ha puesto en valor tanto lanbide como nuestros servicios de formación profesional en definitiva
somos un entorno que cuida la actividad industrial y se demuestra con esta inversión eskerrik asko eskerrik asko

arbitrario bat egin du kasu honetan conoce el tracto temporal señora consejera porque ustedes han sido los protagonistas

ofreciéndosele diez días de plazo para que acuda a prisión la ertzaintza solicita orden de detención inmediata

es la obsesión del departamento con los askeguneak con las herri harresiak con dinámicas de protesta popular pacífica

órdenes injustas la audiencia nacional emite orden de detención a la guardia civil y policía nacional y nuevamente la ertzaintza se entromete se interpone para practicar

familiar de jone señora consejera cumplir órdenes no es policía integral cumplir órdenes que nadie entiende denunciadas por miles de ciudadanos y ciudadanas en busturialdea y por la casi totalidad de sus municipios independientemente del color político de quien los gobierna

no es de policía integral eso es otra cosa no podemos entender qué razones se pueden alegar para la injerencia arbitraria perpetrada por la ertzaintza en el caso de jone

profesionalki horixe besterik ez y esa es la cuestión principal

prácticamente la única que cabe plantearse sobre esta actuación

con profesionalidad y con sentido común para tratar de detener a una ciudadana vasca

nacional en sentencia confirmada por el tribunal supremo a año y medio de prisión condena justa o injusta legítima o ilegítima evitable o inevitable comprensible o incomprensible estos son mis signos de interrogación y ustedes los calificativos que consideren podrán poner

yo no voy a entrar en este debate están en su perfecto derecho tienen que definir definan y defiendan ya ante la ciudadanía su manera de pensar y de proceder

pero desde la responsabilidad política que representan siento que no les interese tener una ertzaintza una policía nuestra nada más que para lo que les interesa pero dejen que la ertzaintza cumpla con su deber con su obligación y con su competencia

va a defender ni va a promover una ertzaintza de la ilegalidad

órdenes superiores que ustedes han decidido asumir acatar a codazos para poderlas cumplir demasiada diligencia para someter para satisfacer ciertamente una orden ilegítima un castigo ejemplar

gobierno jonan fernández denuncia la aplicación excepcional de normas por tribunales excepcionales solicita su abolición pero es que ustedes mientras tanto acatan sus órdenes a pies juntillas y no solo eso ustedes han hecho cambiar una orden

por una detención inmediata ustedes han presentado un informe infecto de la oficina central de inteligencia un informe que da vergüenza

contra la propia jone que ni tan siquiera la guardia civil se atreve ya a hacer

qué es lo que van a hacer ustedes ante el mandamiento judicial de ingreso en prisión

qué van a hacer para que esta ciudadana vasca pueda seguir residiendo en euskadi con normalidad

prefieren que sea la guardia civil la policía nacional quien la detenga pues yo no pues yo no somos la policía integral de euskadi tenemos una competencia y tenemos que desarrollarla y desde luego no tenemos que soportar más estos programas de propaganda política y de exhibición mediática a la que nos están acostumbrando permanentemente

en un nuevo boulevard de donostia ni en el puente de ondarroa

yo lo siento por ella pero este no es el camino para la normalización y la convivencia tampoco es la vía para cambiar las normas ni las leyes

están ustedes en la misma arena política que los demás que todos los demás en este parlamento en el congreso de madrid y en otras instituciones sean consecuentes con la palabra y con los hechos no vale señor arzuaga predicar la insumisión para otros y ser sumiso uno mismo no vale

fachadas del ayuntamiento de donostia o de la diputación de gipuzkoa una vez más pretenden ustedes generar tensiones de inseguridad ciudadana eso es lo que pretenden por qué porque no tienen solución

y es que esta ciudadana vasca no corra el riesgo innecesario de agravar la pena impuesta y confirmada por el tribunal supremo

hace hoy dos años el señor urkullu subió a esta tribuna para ganarse la confianza de la cámara y ser lehendakari

para atender lo que él mismo calificó aquel día como situación de emergencia nacional para afrontar esa descripción trajo su programa marco de actuación aquel proyecto de presupuestos del dos mil trece en el que cifra a cifra

ante esa situación de emergencia recortes en todas las partidas que afectaban al empuje del empleo y a los servicios públicos una respuesta presupuestaria equivocada que obtuvo el rechazo unánime de toda la oposición en este parlamento por lo que acabó devolviendo aquel proyecto al cajón desde entonces

para reforzar las políticas de cohesión social no conocemos ninguna propuesta sería de este gobierno se conocen es verdad ideas ideas a título personal del consejero

la tarea de atender las necesidades más sensibles para los ciudadanos

la vivienda y la protección social ocurrencias

cuando como exige la mayoría de esta cámara debiera de responder con toda la información en su mano y con toda la contundencia a quienes utilizan datos parciales de su propio departamento para seguir azuzando sentimientos de agravio y de exclusión y a los socialistas nos preocupa y mucho esa falta de liderazgo

a alimentar los mensajes de quienes consideran que hay un alto índice de fraude social eskerrik asko pastor jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok señor pastor estoy convencido que tanto

creemos en el sistema de protección social que tiene este país y que estoy seguro también que ambos estaríamos dispuestos a defenderlo ante

sobre nuestro sistema de protección social mire cada vez que he sido preguntado o interpelado sobre esta cuestión aquí en sede parlamentaria en este pleno o en comisión o incluso en los medios de comunicación

de forma indubitada a defender nuestro sistema de protección a procurar lograr su legitimidad ante la ciudadanía como garantía de futuro y de cohesión social creo por lo tanto que mi posición es pública notoria e indubitada creo

seguramente es de hablar demasiado claro eskerrik asko aburto jauna pastor jauna zurea da hitza

usted considera su actuación impecable clara

como acaba de expresar aquí pero nosotros pensamos que usted construye un discurso con el que en cierto modo está engañando a los ciudadanos usted dice defender como nosotros

y además cuenta con herramientas suficientes para hacerlo valer las que les hemos facilitado entre otros los socialistas nuevos ingresos a través de una reforma fiscal que ustedes negaron inicialmente y con ideas concretas donde orientar esos recursos pero a la hora de la verdad señor aburto prefiere arrancar

que se apartan del sistema y que no están avaladas que sepamos por el gobierno

a proclamar que el sistema tal como está puede no ser sostenible

nuevos impuestos cuando probablemente con una adecuada gestión de ese departamento que usted preside

que dan lugar después a campañas demagógicas y nos preocupa muchísimo su mensaje nos preocupa porque viene de quien fue en su momento parte activa

cuando se produjo por cierto el mayor tajo en las prestaciones de ayuda a la dependencia en el dos mil trece

y nadie mejor que usted para poner fin a cualquier utilización parcial de los datos proporcionados a esta cámara a través de diferentes preguntas que se le han planteado la realidad

la confusión de los mensajes que emite y la sensación de descontrol que se deriva del envío masivo y público de miles de cartas de reclamación por pagos indebidos no ayuda precisamente a que se transmita esa sensación a la ciudadanía y no creemos que sea ni por incapacidad ni por torpeza sino probablemente por una medida ambigüedad

este tipo de cosas es lo mismo que propone el alcalde de vitoria

en el fondo usted y él van de la mano usted le proporciona al señor maroto datos parciales

que le permiten seguir con su campaña anti inmigrantes y usted crea el clima social

no tengo palabras señor pastor la verdad es que no las tengo

me ha dejado desconcertado mire yo no he hablado de que mis gestión sea impecable jamás lo he dicho ni hoy tampoco

la información ni manipule mis palabras ha dicho algo muy grave muy grave le pido que se lo piense que engaño a los ciudadanos jamás engañaré a los ciudadanos me podré equivocar pero jamás engañaré

hablando de nuevos impuestos por qué mezcla las cosas por qué mezcla la atención a la dependencia con el sistema de protección social

por qué lo hace señor pastor y luego un poquito de rigor en el dos mil trece señor pastor yo llevaba casi dos años ya

porque en el dos mil once fui a diputado de presidencia y teniente diputado general

sin ninguna duda lo que ha dicho me sorprende las reflexiones del partido socialista mire si me hubieran dicho que ponga cien preguntas

le aseguro que jamás hubiera pensado que podía haberme hecho esta pregunta habla de

por nuestra parte para no aclarar sin margen de dudas la situación real de irregularidades dice en su justificación no lo comparto

interpelado convocado a comisión en este parlamento en muchas ocasiones por no citar

sobre esta materia en concreto cada vez que algunos representantes del partido popular hacían causa

los inmigrantes el fraude en las ayudas sociales y no son

las que dan a entender una sospecha generalizada nada tiene que ver señor pastor y usted lo sabe llevo haciendo las mismas declaraciones desde hace años ya lo explique aquí está incluso recogido en algún documento firmado por su partido

en ninguna ocasión nadie hasta ahora había vinculado las propuestas sobre cómo financiar el futuro de los servicios sociales con la extensión de la sospecha del fraude en estos servicios usted lo ha hecho no yo así que mi respuesta es no no creo que haya sido yo quien consciente o inconscientemente haya contribuido a ello como he hecho hasta ahora seguiré defendiendo

como instrumento de cohesión social de integración de personas en situación y riesgo de exclusión

señor pastor en este camino contar con usted eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

gracias señora presidenta lehendakari buenos días hace un año

del año dos mil catorce desde una visión diferente una visión que se pegaba mucho a la realidad a la realidad que estaba midiendo las diferentes instituciones en las que los recursos

fruto de una grave crisis económica que hacía que los planteamientos respecto a los presupuestos entendíamos nosotros debía cambiar por qué porque ese ajuste esa necesidad de afrontar unos presupuestos desde esa carencia de recursos

no tuviera sentido porque era necesario buscar otros principios era necesario trasladar

un instrumento tan importante como los presupuestos y ahí fuimos trabajando en la necesidad de poner en valor un principio que era el de la estabilidad presupuestaria institucional es decir que pudiéramos lanzar esa imagen de que euskadi tenía una estabilidad en las instituciones que permitiera afrontar el reto del crecimiento y de la creación de empleo con una base sólidas

eso es lo que movió al partido popular a trabajar el año pasado ese es el espíritu con el que este año también hemos querido afrontar el debate de los presupuestos pero

del partido nacionalista vasco mucho nos tememos que algo está cambiando por eso lehendakari le queremos preguntar qué opinión le merece la estabilidad presupuestaria institucional

e institucional y le puedo garantizar que como lehendakari hago todo lo posible para lograrla empezando como corresponde por el gobierno vasco

son firmes y le diré por qué y quiero subrayar además de las posibilidades y condiciones de negociación de cualquier acuerdo presupuestario en cualquier institución

usted recordara que en mayo del pasado año y no solamente en mayo del pasado año sino que en marzo del pasado año presenté un documento

de la situación a todos los grupos parlamentarios ese documento recoge compromisos económicos fiscales y sociales como base para una política consensuada segundo la estabilidad se basa en una estrategia compartida hemos firmado un acuerdo para el empleo y la reactivación con una

hasta el año dos mil dieciséis un acuerdo pnv partido socialista de euskadi además de un acuerdo también sobre fiscalidad al que ustedes se sumaron

y tercera clave el gobierno ha acreditado el cumplimiento de sus acuerdos presupuestarios de forma previa a negociar el presupuesto del siguiente año

y cuando se aprobó el presupuesto de este año nosotros somos muy conscientes de que no recibíamos un cheque en blanco todo lo contrario

una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento hemos cumplido lo pactado un paso imprescindible para volver a pactar yo no sé si en otras instituciones

entendíamos que tanto ustedes como nosotros compartíamos que era un bien en sí mismo el acuerdo

estabilidad en todas las instituciones pero porque creíamos nosotros por lo menos es que yo pensábamos que compartíamos que era necesario

porque compartíamos un modelo económico porque entendíamos que era clave en esos momentos mandar ese mensaje y así lo plasmamos en ese documento que firmamos porque entendíamos que los presupuestos deben tener una función de servir como instrumento de política económica

pensábamos que también era importante para minorar paulatinamente el déficit público

además constatábamos que el hecho de contar con una estabilidad presupuestaria institucional permitía adecuar las competencias de cada administración de cada institución

la pregunta es qué ha cambiado por qué ahora ya esto no se sirve por qué ahora para el partido nacionalistas vasco esto ya no sirve

es verdad que hay unos datos que nos hacen pensar que está mejorando gracias al esfuerzo de los ciudadanos pero está ahí lehendakari qué es lo que ha cambiado mire lo que yo creo que ha cambiado es que ahora hay otras

por encima de los intereses de los ciudadanos de esa deseada estabilidad institucional lo que está poniendo es sus intereses partidistas

y no nos parece serio porque nosotros sí nos creemos que esa estabilidad presupuestaria institucional es necesaria para afrontar la crisis económica eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarkiburu andrea señora quiroga veo que sigue usted preguntándome por una institución o por unas instituciones que no es el gobierno vasco me pregunta usted qué es lo que ha cambiado y qué es lo que ha cambiado para partido nacionalista vasco se ha hecho usted la pregunta qué lo que ha cambiado para partido nacionalista vasco como consecuencia de la actitud del partido popular

no me corresponde a mí juzgar la forma de proceder de los partidos políticos y menos la actitud del resto de las instituciones en el caso del gobierno y el presupuesto del próximo por parte del gobierno usted cuenta con la información y una propuesta concreta las puertas del acuerdo están abiertas y usted lo sabe bien hablo de mi responsabilidad durante este año nosotros hemos dado prueba de nuestra apuesta por la estabilidad en todas las instituciones públicas le citaré ejemplos que conoce bien acuerdos unánimes en el consejo vasco de finanzas acuerdos de inversión tras la relajación del objetivo del déficit planes comarcales de empleo

estrategia de emprendimiento en todos han participado las tres diputaciones forales también por lo tanto el partido popular el espíritu la voluntad y la práctica del gobierno vasco están acreditados pregúntese usted por aquello que responde a la responsabilidad valga la redundancia del partido que usted dirige

es un hecho indiscutible que cada vez que se habla de corrupción política el partido nacionalista vasco

no solamente en este parlamento sino fuera de este parlamento en los diferentes debates que hemos mantenido

lo cierto es que en cuanto alguien habla de corrupción política el partido nacionalista vasco se pone muy nervioso y se pone a la defensiva usted

en este parlamento que su gobierno y su partido político están limpios de corrupción política e insistió en la idea de que la sociedad vasca tiene una cultura diferente a la del resto de españa

sean menores que en otras zonas de españa nosotros no dudamos de que la sociedad vasca es decente el asunto es que

se le acumulan asuntos turbios algunos de los cuales están en los tribunales como este por el que le pregunto lo cierto es que el pasado día veintisiete de noviembre en el ayuntamiento de leioa se aprobaron las conclusiones de la comisión de investigación abierta en diciembre del dos mil doce y relativa

en leioa el dictamen ha sido contundente y reprueba públicamente al exalcalde de la localidad y actual director de metro bilbao señor

miembros del partido nacionalista ambos cargos del partido nacionalista vasco cuestiones como el procedimiento de adjudicación los principios de igualdad y transparencia la valoración de las ofertas o la alteración de precios en concursos y subastas públicos han estado presentes

ya digo ha concluido señalando indicios muy graves de irresponsabilidad e irregularidad sobre algunos de los capítulos mencionados

de los cargos del partido nacionalista vasco la oposición en este ayuntamiento ha reprobado la gestión del partido nacionalista vasco ha denunciado que la operación más importante de la historia de leioa por su valor y simbolismo no solo fue irregular

detectados en el proceso de contratación sino porque semejante presupuesto puso en peligro de forma temeraria la viabilidad económica del ayuntamiento la oposición también censuró que el partido nacionalista vasco no solo no haya colaborado en la investigación en esa comisión de investigación sino que haya puesto todo tipo de trabas existen por lo tanto indicios de corrupción también en este asunto

lehendakari este es el compromiso del partido nacionalista vasco

qué es lo que tiene que decir en relación a esta cuestión pensamos que estamos hablando de un asunto extraordinariamente grave y usted supongo que tendrá algo que decir

legebiltzarkideok señor maneiro están ustedes mezclando y confundiendo intencionadamente ámbitos institucionales diferentes momentos diferentes

corresponde a los órganos municipales del ayuntamiento de leioa abordar en las instancias que en su caso entiendan oportunas las cuestiones que resulten de competencia y responsabilidad municipal

lehendakari posibles casos de corrupción política interesa que sean tratados en este parlamento aquí es donde tiene que hablarse también de posibles casos de corrupción política vamos a pedir la comparecencia del funcionario que denunció amenazas de un cargo del partido nacionalista vasco el tema está ya en la fiscalía y veremos cómo acaba

al menos miren el próximo miércoles el partido nacionalista vasco de leioa ha convocado a todos sus afiliados para explicar a sus propios afiliados este asunto nosotros esperamos que el partido nacionalista vasco al menos a sus afiliados les cuente la verdad en todo caso nosotros vamos a seguir trabajando para saber

maneiro en contestación a lo que nos pregunta y a lo que se refiere al ámbito de trabajo y al ámbito de control del gobierno vasco esta es una sesión de control al gobierno vasco creo recordar en el periodo del señor arruabarrena como director gerente de metro bilbao menos de dos años lleva el metro de bilbao

que es lo que a nosotros y a mí en particular me toca tener en consideración

a través de diversos acuerdos con la representación sindical que han supuesto una normalización de las relaciones laborales en la empresa

que se habían reducido o extinguido por la anterior dirección se han reducido los gastos en materia de energía gastos comerciales de consultoría gastos corrientes en general la fiabilidad del servicio de metro bilbao es de un noventa y nueve coma ochenta y seis por ciento la puntualidad de los trenes es un noventa y ocho coma veintitrés por ciento se ha logrado una cifra récord en metro de absentismo por enfermedad

en definitiva estos son los datos objetivos que en lo que a mí respecta avalan la gestión

al frente de la sociedad metro bilbao eskerrik asko

honakoa esaten du confebask tiene un especial interés en este asunto es sobradamente conocida la estrategia del sindicato mayoritario en el país vasco

a la que está arrastrando además al tercer sindicato lab con quien suman cerca del sesenta por ciento de la representatividad sindical

con éxito que exista y se practique por el resto de agentes dicho diálogo social y dedican buena parte de sus esfuerzos a cuestiones

como todo lo referido al tren de alta velocidad o que solo muy colateralmente tienen que ver con la acción sindical iniciativas legislativas sobre cláusulas sociales

por supuesto que dichas organizaciones pueden libremente dedicarse a lo que estimen más oportuno pero no deberían investidas de lo que realmente no son

poder condicionar e incluso anular la actividad propia de las organizaciones empresariales y sindicales que sí lo son

bertan partehartzeari creo que no cabe duda señora arrondo de cuál ha sido la opinión de este gobierno

surgen dudas por diferentes ámbitos y digo lo de supuesto porque mientras unos afirmaban otros negaban y hasta donde yo sé esas eran las manifestaciones que había

en esta tesitura pensamos que nuestra obligación era mantener la convocatoria de la mesa de diálogo porque entre otras razones creemos que es allí donde han de debatirse estas polémicas si es posible solucionarlas el día cuatro de diciembre se celebró la primera mesa de diálogo tripartito de esta legislatura diálogo respecto

de expresarnos también en comparecencias anteriores lo que este gobierno hizo fue modificar el orden del día de la reunión de la mesa de diálogo tripartito e introducir un nuevo punto el primero a tratar después de la constitución y apertura de la mesa decía así declaración de la mesa en relación al borrador

es decir llevamos el debate al lugar que creíamos conveniente es decir en esa reunión de la mesa de diálogo tripartito en la que estuvimos presentes el gobierno representantes de confebask de ugt y a la que no acudieron ni ela ni lab

se trató este asunto con carácter preferente por nuestra parte insistí en todos y cada uno de los conceptos que ya había expresado de forma pública

se alcanzó entre todos los presentes un acuerdo que consistió en esta declaración en relación a la polémica surgida por la tramitación de alegaciones

deseamos dejar claras dos cuestiones uno reconocemos la dimensión socio laboral y socio política de las organizaciones empresariales y sindicales siendo ellas mismas soberanos para definir su perímetros de actuación

de los medios típicos de acción que le son propios y les diferencian de otro tipo de asociaciones en función de los requerimientos normativos y dos

a aquellas que no lleven a cabo el ejercicio de los medios típicos de acción

aprobamos remitir el acuerdo al ministerio de empleo y seguridad social se aprueba también que quien lo remita sea la propia mesa es claro es público y es notorio de lo expuesto con anterioridad queda clara la postura de este gobierno lo que pensábamos hacer ya se ha hecho tomar posición hacerla pública trasladar este asunto a la mesa de diálogo tripartito

que han deseado participar dejemos claro cuál es nuestro pensamiento al respecto tomar posición y hacer pública la misma como he dicho mis manifestaciones creo que no dejan el menor lugar a dudas si el documento fuera cierto era una barbaridad constituía un tema grave y debía aclararse con absoluta rotundidad

el orden del día previsto inicialmente fue modificado y fue modificado

allí la discusión para que la postura fuera clara por todas las partes como elemento necesario para continuar con la mesa de diálogo social

de la mesa por tratarse de la primera reunión de la misma con lo cual creemos que se resaltaba su importancia se resaltaba su carácter previo

constituyó la declaración que hemos leído y que a nuestro modo de entender no deja dudas dos liderar la declaración el contenido de la declaración insisto no ofrece al menos a nuestro modo de ver lugar a dudas todos los presentes gobierno patronal

que pueda excluirse del registro de organizaciones empresariales y sindicales a aquellas que no lleven a cabo el ejercicio de los medios típicos de acción

que establece el propio decreto además esta declaración ya ha sido en estos momentos trasladada por medio de una certificación del secretario técnico de la mesa al órgano que pidió opinión y posicionamiento tanto a las distintas comunidades autónomas como a los agentes sociales así el trabajo

hemos continuado porque para este gobierno para este gobierno la cuestión planteada constituía lo que podíamos denominar el suelo del diálogo social había que partir de un suelo y con lo que había ocurrido esta declaración

esto es el reconocimiento de las partes de lo que representan

o no las acciones que democráticamente les corresponden entre otras la negociación colectiva

los conflictos colectivos y la participación institucional dejando claro que debían ser las propias instituciones los propios agentes sociales quienes democráticamente y legítimamente decidan cuál es su estrategia

y no teniendo otra opción que respetar la misma por parte del resto de agentes y por parte del gobierno así lo hemos hecho así lo seguiremos haciendo en un futuro

e intentar compartir un diagnóstico de la situación fijar los objetivos conjuntos que deberíamos tener y ver las condiciones de trabajo en el conjunto de los trabajadores en euskadi

y asumimos la responsabilidad con conocimiento pleno de las dificultades incluso asumimos la responsabilidad

un gobierno de coalición y después de que eh bildu presentara una candidata a lehendakari que sacó menos votos que

en el uso de la palabra este gobierno se presentó insisto con un programa concreto y transparente las seiscientos veinticinco o seiscientos veintisiete iniciativas

este año espero que aprobemos los planes estratégicos comprometidos que configuran nuestra apuesta por la nueva euskadi dos mil veinte antes del próximo inicio de periodo de sesiones basada en el desarrollo humano y crecimiento sostenible

krisia hasi zenetik lehenengo aldia dela hau gertatzen dena estos dos años el gobierno ha avanzado en los tres ejes de actuación y comienzo

por la prioridad económica la prioridad de este gobierno le recuerdo que hace dos años euskadi se encontraba en recesión y hoy estamos en crecimiento

y hoy nos encontramos en el quinto trimestre seguido de crecimiento este año crecemos el uno por ciento y el que viene esa es nuestra expectativa el uno coma siete por ciento y más si fuera posible mejor obviamente euskadi venía perdiendo empleo desde el inicio de la crisis hoy crece en las contrataciones y se crea empleo

inscritas en lanbide en diciembre de dos mil trece bajaron a ciento sesenta y siete mil

el número de puestos de trabajo ha tenido un incremento interanual del cero coma cinco por ciento el más elevado de los últimos siete trimestres como consecuencia de la política del gobierno no pero también usted dirá que es insuficiente yo digo que vamos a crear empleo neto por primera vez desde el inicio de la crisis

y que se corresponde con lo que es el mensaje central de este gobierno dos de cada tres euros y esto es algo que es comprobable en los presupuestos se destina al presupuesto social

hemos mantenido el empleo público estructural ahora podemos ofrecer podemos plantear ofertas públicas de empleo con garantías

apoyando a la internacionalización y la innovación no sé qué me viene a hablar del plan de ciencia tecnología innovación

está citado para el lunes para aprobar el plan vasco de ciencia tecnología e innovación estamos asentando las bases de la nueva economía del futuro vamos a seguir apoyando la economía real este es el eje de nuestra política de estímulo es el modelo que defendemos reactivación económica

hoy euskadi cuenta con indicadores que nos permiten mirar al futuro con confianza el mundo económico puede tener confianza vamos a seguir apoyando la inversión y el crecimiento porque esta es la única forma de crear empleo que es nuestro objetivo central bigarren ardatza bakea eta bizikidetza da lehenengo egunetik gauzak

las cosas claras desde el primer día principios y valores claros

informe de vulneración de derechos humanos instituto de la memoria

memoria histórica proyecto educativo trabajo con el consejo de la juventud con las universidades el último informe sobre atentados las dieciocho iniciativas también en el ámbito de paz y convivencia están en marcha

y la ilusión de legar una sociedad en paz y convivencia una sociedad señora beitialarrangoitia con principios y valores en la que la violencia no tenga espacio

y reconozco que sí que tenemos que seguir avanzando pero reconozca que hemos avanzado

se crea empleo contamos con un plan de paz y convivencia que se está cumpliendo les hemos ofrecido una propuesta clara les estamos esperado señora beitialarrangoitia y sobre todo contamos con dos años más para seguir avanzando y construyendo país también desde este parlamento nosotros vamos a seguir en la tarea

muchas gracias presidenta lehendakari defender el diálogo social no es invocarlo es practicarlo

ejercerlo y en este asunto en la elaboración de la ley del empleo público su gobierno ha mostrado poca cintura y poca sensibilidad en lo social y en lo competencial tan es así que ustedes han tenido que admitir la necesidad de reformar el texto aprobado inicialmente unilateralmente y los socialistas nos tememos que en esta legislatura sea de las tareas pendientes de la misma se disponían ustedes a regular una materia que afecta a decenas de miles de trabajadores públicos para adaptar sus funciones a las necesidades de los ciudadanos y pasan por alto un detalle que les parece menor saber qué piensan

de los trabajadores al respecto ya sabemos que los anteproyectos tienen sus correspondientes trámites de audiencia posteriores a la elaboración del borrador

se trata de la falta de sensibilidad no debería sorprendernos

tampoco debería este gobierno sorprenderse por la altísima conflictividad en los servicios públicos durante este otoño que no es más que el reflejo de esta falta de tacto y oído del que le hablamos porque esta conflictividad no es porque determinados trabajadores quieren mantener sus privilegios no como insinúan miembros de este ejecutivo

restricciones derivadas de la crisis han visto cómo su gobierno no les busca para encauzar los servicios públicos y los que prestan servicios

la ertzaintza o radio vitoria diálogo social

diálogo social es mantener siempre la puerta abierta consultar con los representantes de los trabajadores aquello que les afecta y esta ley les afecta en todo derivado de ello lo que ha ocurrido con la ley de empleo público que a falta de diálogo social ha sumado una renuncia abnegada al ejercicio de competencias propias

a lo dictado por el gobierno de rajoy la falta de negociación con la representación sindical en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de empleo público vasco es un clamor público y ustedes no han sabido entender la trascendencia de una ley que afecta a miles de trabajadores autonómicos forales y locales

este gobierno opta por la sumisión a rajoy porque este anteproyecto hace enteramente suya la ley de empleo público estatal con pocas variaciones respecto a la misma

total a las normas estatales y tiene una gran trascendencia dado que va a regir las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas de la administración

así como también de todas las sociedades dependientes de ellas además puede ser de aplicación de forma parcial cuando así lo disponga su legislación o normativa específica

al personal docente universitario con condición de funcionario o personal laboral de la universidad del país vasco

en el personal al servicio al parlamento vasco y en el personal de juntas generales de los territorios históricos sin embargo a pesar de la trascendencia

una negociación para la elaboración del anteproyecto de ley de empleo público con la representación sindical porque no se puede llamar así al monólogo al que estamos asistiendo

a un monólogo nunca se le puede llamar negociación y esto a juicio de nuestro grupo parlamentario los socialistas vascos es grave pero este no es un caso aislado desgraciadamente esta es la tónica general que se está llevando a cabo por el actual gobierno vasco

el nueve de diciembre tuvimos la oportunidad de escuchar en su comparecencia ante la comisión de instituciones seguridad y justicia del parlamento vasco a los representantes de los sindicatos

para darnos su opinión a los parlamentarios sobre el proyecto de ley de administración pública vasca

destacaron en sus comparecencias ambos sindicatos la falta de negociación con la representación sindical también en la elaboración del texto del proyecto de ley de administración pública vasca de este proyecto de ley se informó según indicaron en abril de este año la representación sindical y lo único que ha existido en su elaboración

un monólogo es decir han informado del proyecto pero sin que haya existido una negociación con la representación sindical en su elaboración esto no puede ser la tónica general que siga el gobierno vasco en la elaboración de sus leyes no puede serlo y menos en leyes de envergadura como son la ley de administración pública y la ley de empleo público vasco no quiero

entrar en el fondo de lo regulado en el anteproyecto de ley de empleo público vasco esa no es la finalidad de la interpelación que hoy traemos desde mi grupo parlamentario al pleno

a la necesidad de llevar a cabo una negociación real con la representación sindical en la elaboración del texto del anteproyecto de ley de empleo público vasco

negociación a convocar una reunión el once de septiembre de este año y presentar en la mesa de función pública el texto reunión donde los representantes asistentes

rechazaron el texto ante esta situación el cinco de noviembre del dos mil catorce se reunió de nuevo la mesa de función pública en vitoria durante la cual se discutieron cuestiones referentes al anteproyecto de ley de empleo público

en representación del gobierno vasco el vice consejero de función pública don andrés zearreta y la representación sindical

y lab aunque los representantes de este último sindicato abandonaron la mesa tras su apertura sin hacer aportaciones o alegaciones de fondo en la misma durante esa reunión por parte del sindicato ela se presentaron doscientos alegaciones

estructura retributiva clasificación profesional de los empleados públicos euskera

pero solo pudieron hacer un resumen de esas alegaciones en dicha reunión se manifestó por parte del ejecutivo que se presentaría un nuevo borrador en el plazo no superior a un mes

y desde el ejecutivo señalaron que se tendrían en cuenta algunas de las aportaciones presentadas por los representantes sindicales en la última reunión a la que he hecho referencia ha pasado ya la fecha prevista de un mes era el cinco de diciembre estamos a doce de diciembre

de sí se han tenido en cuenta las alegaciones o no o de si se ha modificado el texto del anteproyecto de ley de empleo público vasco pero lo que es una evidencia a gritos no ha existido un debate de esas enmiendas entre el gobierno vasco y la representación sindical es decir no ha existido una verdadera negociación que es lo que se debe

de una ley de empleo público vasco y el volumen de funcionarios y de personal laboral al que puede afectar la elaboración de dicho texto habría de

que no se está dando hasta el momento presente por todo ello

le pregunto en esta interpelación si se plantea el gobierno de una verdadera negociación en la elaboración del texto del anteproyecto de ley de empleo público vasco o sin embargo van a continuar como hasta ahora negociando o más bien recogiendo solo alegaciones

señora sánchez había formulado usted una interpelación

al anteproyecto de ley del estatuto del empleado público vasco y preguntaba concretamente sobre el propósito del gobierno en relación con la negociación o el planteamiento de una negociación real con la representación del personal a propósito de la tramitación de ese anteproyecto de ley he visto que en su primera intervención ha ampliado el perímetro de la interpelación

la negociación colectiva ha planteado otras dos cuestiones primero ha hablado de otra ley de la ley de administración pública vasca

que tiene que ver con la pretendida o presunta subordinación de los contenidos del anteproyecto

estatal que usted ha identificado como la normativa de rajoy le quisiera recordar solo

no voy a entrar en esta cuestión y no tenemos un tiempo ilimitado para hablar sobre el tema

que la normativa básica del estado en el ámbito de la función pública básicamente contenida en este momento en el estatuto básico del empleado público no es de rajoy es del año dos mil siete es la normativa aprobada en la época de

me extraña por tanto que por parte del partido socialista primero se cuestione

que lo haga eh bildu es normal pero que lo haga el partido socialista no es tan raro y llama mucho más poderosamente la atención todavía el hecho de que la normativa básica

a la que se pretende que no se subordine o que no respete la normativa autonómica vasca sea además dictada por un gobierno socialista esto llama mucho la atención

una portavoz del partido socialista en cualquier caso como la interpelación insisto a parte de estas consideraciones tangenciales que ha hecho usted

referencia central o nuclear en mi intervención

hacer un relato de los hechos de lo que ha llevado a cabo este gobierno en relación con la representación del personal durante la tramitación del anteproyecto de ley del empleado público vasco y para intentar demostrarle no solamente que es propósito del gobierno llevar a cabo una negociación real efectiva y verdadera en relación con este anteproyecto de ley además sino además que esa negociación se está desarrollando ya

una realidad que esta teniendo lugar en estos momentos a través de los mecanismos que están previstos en la ley para

con la representación del personal no solamente porque lo exige la ley

que va a establecer una regulación de la ordenación de la función pública y por tanto con arreglo

la negociación colectiva es obligada no solamente porque además del estatuto básico del empleo público

de este consejero que es también empleado público aunque hace ya muchos años que no ejerce directamente como tal que es convicción de este consejero el de no impulsar una norma de carácter general

relacionada con la ordenación de los recursos humanos de las administraciones públicas sin contar con la opinión de la representación sindical

no solamente porque lo exige la ley sino porque es convicción personal del consejero el que eso tenga que hacerse así

y hay una amplia jurisprudencia en este sentido no significa que necesariamente tenga que producirse acuerdo eso sí también la jurisprudencia exige que la negociación sea no aparente no un mero paripé sino que sea real y auténtica que tenga contenidos y el indicador incuestionable que pone de manifiesto que acredita

y cuándo es mera ficción el indicador infalible es

cambios en los contenidos del texto sometido a la misma

cuándo se produce esta negociación usted me hablaba de que el texto ha sido elaborado unilateralmente por parte del gobierno es que claro este gobierno este parlamento en el que estamos que

una ley que regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general

en el que se tiene que llevar a cabo la negociación con la representación sindical cuando el proyecto ley requiera esa negociación

que es de veintidós de diciembre del año dos mil tres dice que esa negociación se produce

y juntamente con los trámites de audiencia consulta y de información pública y esto es exactamente lo que ha hecho el gobierno cumplir una previsión legal aprobada por este parlamento a tal efecto le voy a describir cuales son los pasos que hemos dado hasta la fecha bien el texto que está en circulación en este momento que fue remitido

sindical sale no unilateralmente del gobierno sino de un equipo de trabajo que se constituyó en septiembre del año dos mil trece integrado por

representantes de los tres niveles institucionales que articulan la comunidad autónoma representantes del gobierno de las tres diputaciones forales

el grupo de trabajo de composición eminentemente técnica integrado por representantes de las instituciones responsables de gestión de personal con formación jurídica todos ellos desarrolla su trabajo hasta el mes de abril del año dos mil catorce una sesión aproximadamente por mes

suscribo yo la orden de inicio el trece de mayo del año dos mil catorce y la aprobación previa del texto tiene lugar el uno de septiembre del año dos mil catorce

inmediatamente después abrimos un trámite de audiencia en el que se da opción a participar y hacer alegaciones a prácticamente todas

decir en relación con este asunto mantenemos reuniones sectoriales y bilaterales con todas las formaciones sindicales de carácter sectorial es decir con los que no tienen representación directa en la mesa general con erne con esan con stee eilas

y con el sindicato médico y el once de septiembre efectivamente se reúne la mesa general

del anteproyecto de ley a la representación sindical en esa mesa general donde las centrales sindicales que forman parte de la mesa general reciben el texto lógicamente con críticas normal ocurre con casi todos los proyectos de ley que establecen o abordan una regulación general de la función pública pero la mayoría de ellos se comprometen a participar en el proceso y hacer aportaciones además de esto el gobierno hace un esfuerzo de información y de comunicación a todos los empleados públicos en relación con los contenidos del anteproyecto celebra varias reuniones directamente con los empleados públicos en la sede central del gobierno vasco en la asamblea

y en las delegaciones de los tres territorios y en contacto directo con los propios empleados públicos no ya con sus representantes sino con los propios empleados públicos y se celebran durante el mes de octubre reuniones bilaterales con los sindicatos que sí tienen reunión sí tienen presencia en la mesa general además de la información que se cursa

presentes en la mesa general el cinco de noviembre usted ha hecho referencia a esta reunión ha hecho una referencia parcial ilimitada pero

y en esa reunión de la mesa general algún sindicato presenta ya alegaciones por escrito y la mayoría de los restantes se comprometen a presentarlos también por escrito en el próximo mes

de representación y alegaciones por parte no solamente de los sindicatos sino de todos los organismos entidades y personas que habían sido invitados para ello se pueden contabilizar en este momento mil doscientos cuarenta y uno alegaciones

alegantes sindicatos los sindicatos presentan cuatrocientos veintisiete alegaciones

según el informe que me han pasado de función pública ela ciento treinta y siete lab ocho ccoo ciento cinco ugt sesenta y ocho satse cuarenta y siete sme cuarenta utese seis sae uno y stee eilas bost bien el plazo se amplió para la resolución de solicitudes

el uno de diciembre hace exactamente once días y lógicamente este magno trabajo

poco margen de tiempo por tanto estamos analizándolas la previsión del gobierno es contestar a todas incorporar muchas modificaciones algunas de ellas

se explicitó claramente allí no solamente la voluntad del gobierno de examinar con criterio abierto y receptivo las alegaciones que se hacen si no que se comprometieron ya muchas modificaciones

por tanto modificaciones reales ya se han producido en el contexto de la ley

responder a todas las alegaciones y avanzar con el proceso negociador eskerrik asko

señor consejero aunque la interpelación la había dirigido al señor lehendakari

con usted yo estoy de acuerdo que por supuesto tienen que respetar la norma general hay que hacerlo siempre

de distintas leyes en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas lo primero que hay que hacer es respetar esas leyes

de respetarlas y cumplirlas y formas de elaborar un texto de una forma más propia sin que sea una reproducción de lo que se ha recogido

no se ha contado con la opinión de los sindicatos simplemente como usted ha manifestado se han presentado unas alegaciones esas alegaciones pueden ser extensas

para estudiar esas alegaciones no le digo yo que no pueda ser así pero una cosa es recibir las alegaciones y otra cosa que es lo que estoy yo manifestando hoy aquí

después con los sindicatos para poder llegar a un texto consensuado dada la gran trascendencia e importancia que tiene esta

abierta a la participación y cercana a la sociedad que cuente con las condiciones de trabajo dignas que ha de huir

garantizándose un sistema de acceso a la administración vasca basado en la capacidad

en condiciones de igualdad este ejecutivo a nuestro juicio está negando el derecho a la negociación colectiva a la representación sindical y no lo décimos solo nosotros es que nosotros hemos hablado con los sindicatos y todos los sindicatos manifiestan que se está produciendo esa falta de negociación con todos ellos y ha efectuado un nivel de recortes

hay cuestiones de gran calado dentro del articulado de este anteproyecto entre otros por ejemplo el establecimiento de topes salariales marcados por madrid que deberían ser objeto de negociación seria con la representación sindical deberían ser fruto

y no impuestos si queremos que la reforma perdure en el tiempo por eso mi grupo los socialistas vascos consideramos que es importante que se cuente con la voluntad real de llevar acabo acuerdos que

y consecuencia de toda negociación pero por lo menos hay que empezar y llevar a cabo esa verdadera negociación y proceder a elaborar un calendario

que permita traer a este parlamento una ley consensuada con la representación sindical empiecen a fomentar el diálogo social real y efectivo

referente al mandato parlamentario en el empleo público que no están sabiendo gestionar el diálogo social en las mesas sectoriales y de función pública

es un claro ejemplo de ello este año el departamento de administración pública y justicia ha llevado a cabo un proyecto el de la ley de administración pública que he puesto como ejemplo porque hace muy pocos días los sindicatos ponían sobre la mesa de la comisión

su percepción y su manifestación de falta de negociación en la elaboración del mismo y tienen ahora un anteproyecto

real con la representación sindical tampoco aunque el ámbito de negociación pueda ser diferente en los dos casos eso es una realidad

que se elabore un calendario de negociación del anteproyecto de ley de empleo público vasco y que se cumpla y que la ley de empleo público vasco llegue a este parlamento consensuada o negociada con la representación sindical de los trabajadores en la mesa de función pública dada la gran importancia y la gran trascendencia

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora sánchez como veo que en esta segunda intervención

en mi primera referencia la ley de administración pública vasca

a decir que el anteproyecto se limita a reproducir es mera reproducción del estatuto básico del empleado público

y otra cosa es que se limite el texto a una mera reproducción del texto básico del estado cosa que es absolutamente falsa no sé si usted ha comparado los dos textos hay algunos aspectos en los que la coincidencia puede producirse pero tienen poco que ver un texto con el otro se respeta

pero la diferencia entre los textos es evidente me cita de nuevo la ley de administración pública vasca le recuerdo que el estatuto básico del empleado público aprobado en el gobierno en la época de zapatero por lo tanto supongo que lo compartirá

no están sujetas a la negociación colectiva las cuestiones organizativas están al margen de la negociación colectiva los sindicatos lo quieren negociar todo también

no tienen derecho a participar en la negociación relativa a esas cuestiones por tanto las cuestiones organizativas

no está sujeta a la obligación de negociación colectiva con los sindicatos otra cosa es que los sindicatos hayan tenido todo el derecho del mundo a hacer alegaciones también durante la tramitación del anteproyecto y lo han tenido y francamente he encontrado muy pocas alegaciones de los sindicatos en relación con la ley de administración pública vasca y han venido muchas alegaciones pero los sindicatos no se han molestado

hayan podido darle importancia a un texto que mientras se tramitaba y tuvieron ocasión de hacer alegaciones pues sencillamente no las hicieron bueno mire

hay una sentencia reciente de enero de este mismo año del tribunal superior de justicia de castilla la mancha que anula dos donaciones de puestos de trabajo de la comunidad autónoma castellano manchega porque se aprobaron sin negociación por tanto esta

y es una sentencia que refleja muy claramente que la negociación tiene que tener contenidos reales tiene que producirse

pero como muestra inequívoca de que la negociación está teniendo ya lugar yo le he dicho que en la última reunión de la mesa general la del cinco noviembre

un número no desdeñable de preceptos del texto original nada menos que el doce el cuarenta y seis el cuarenta y siete el cuarenta y nueve el cincuenta y tres

ciento noventa y cuatro la disposición adicional cuarta y además se acordó incorporar una nueva a instancia de los sindicatos una nueva disposición adicional para

el texto está siendo ya objeto de modificaciones por tanto nadie va a poder decir en relación con el mismo que no se haya producido que no se esté produciendo una negociación real y con contenidos y que lo que está teniendo lugar sea un mero paripé por tanto las alegaciones han sido muchas

hace tan solo once días que han llegado todo esto no se puede procesar en dos días no se puede procesar si se quiere analizar con rigor con seriedad con espíritu constructivo y receptivo todo lo que están aportando las centrales sindicales hace falta tiempo yo le he dicho que durante el mes de enero vamos a estudiarlas y vamos a responder a todas las alegaciones

la negociación como usted creo que lo ha hecho notar también no necesariamente tiene que desembocar en un acuerdo o en un texto consensuado hace

con un escaso nivel de consenso con los sindicatos también hasta tal extremo que las alegaciones que hicieron los sindicatos fueron mucho menores en número

probablemente porque no tenían ningún interés o porque francamente tenían poca esperanza en que fueran a ser considerados yo me comprometo a traer el proyecto de ley a esta cámara cuando sea proyecto de ley con un grado de consenso con los sindicatos

no menor del que el gobierno anterior trajo a la cámara

voy a seguir por tanto el modelo de referencia que ustedes han marcado con aquellas conversaciones tan intensar y aquellas negociaciones tan fuertes que tuvieron con la representación sindical

sí gracias presidenta señor lehendakari el pasado viernes se presentó el informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados

y dos mil catorce caso vasco tal y como se este informe a nosotros nos interesa saber qué va a hacer a partir de ahora el gobierno para tratar de que se haga justicia y se produzca la necesaria reparación que exigen las víctimas del terrorismo y de ahí nuestra interpelación

una vez conocido el informe sobre atentados terroristas sin resolver pero antes de que me responda a esto quiero decirle algunas cosas

éeste es un asunto que nos interesa mucho hemos presentado en los últimos años tanto en el congreso de los diputados como en este mismo parlamento distintas iniciativas para reclamar a los poderes públicos que hicieran todo lo posible para tratar de esclarecer lo antes posible esos atentados cometidos

pendientes de clarificación y hemos venido diciendo y repitiendo ya digo tanto en el congreso de los diputados como en este parlamento más bien solos que

recordar no solo que eta debe disolverse incondicionalmente y para siempre sino recordar también que siguen estando pendientes de resolver nada menos que trescientos veintiséis crímenes de la banda nosotros hablábamos de trescientos veintiséis

este es el dato que dio la fundación de víctimas del terrorismo perfectamente explicado en el informe que en su momento elaboró y por lo tanto sobre este informe hemos venido preguntando y realizando ya digo distintas iniciativas parlamentarias

y hemos venido reclamando durante todo este tiempo que tanto los representantes políticos como el conjunto de las administraciones públicas deben hacer todo lo posible y de manera absolutamente prioritaria para que todos estos crímenes sean y he repetido en más de una ocasión que no puede ser que los partidos políticos vascos presten más atención a los presos de eta que a las víctimas del terrorismo

en ese informe sostiene que más de un cuarenta por ciento de asesinatos han salido gratis a sus autores y a eta según

existen a día de hoy trescientos veintiséis víctimas mortales sin sentencia de autor material

estaría pendiente de clarificación y de resolución y he citado en más de una ocasión también una frase del escritor jorge martínez reverte cuando decía que muchos de los que defienden con tanto

la reinserción de los presos de eta se olvida que hay aún trescientos veintiséis asesinatos de eta pendientes de ser resueltos es decir hay miles de personas en españa

mató a sus familiares y hemos venido también reclamando y recordando la necesidad de condicionar el acceso a planes de reinserción o la obtención de beneficios penitenciarios por parte de los presos de eta

que son los que establece la legalidad vigente en concreto desvinculación definitiva y pública de la banda petición de perdón público a las víctimas y a la sociedad por sus actos asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración con las autoridades y la justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos y hemos venido dando especial importancia a este último requisito

de que los presos de eta colaboren con las autoridades y la justicia para la resolución de los delitos terroristas no resueltos que deban cumplir

claramente en la ley para poder obtener beneficios penitenciarios y lo cierto es que hemos estado prácticamente solos en la defensa de cumplimiento estricto de en concreto este requisito ahora del informe que ha sido presentado por el gobierno vasco un estudio

del ejecutivo autonómico y que ha sido coordinado por el periodista carlos fonseca según este informe contabilizan novecientos veintisiete asesinatos desde mil novecientos sesenta hasta la actualidad por grupos terroristas relacionados según se dice con el caso vasco de las novecientos veintisiete víctimas que se ha cobrado el terrorismos desde mil novecientos sesenta ochocientos cuarenta y ocho según se dice fallecieron a manos de eta y aquí en fin digamos que

otros datos dados en su momento por el propio gobierno de españa que hablaba en su momento de ochocientos veintinueve asesinatos cometidos por eta o por lo que distintos autores han plasmado o plasmaron en su momento en el libro vidas rotas que hablaban de ochocientos cincuenta y ocho los asesinatos cometidos por eta aquí de novecientos veintisiete víctimas que se habría cobrado el terrorismo desde mil novecientos sesenta de las cuales ochocientos cuarenta y ocho

víctimas a manos de eta el veintitrés por ciento de estos atentados no han sido esclarecidos según dice el informe por lo tanto este informe hablaría de ciento noventa y siete

de esclarecer en un sesenta y cuatro por ciento de los casos ha recaído una sentencia contra los autores los asesinatos terroristas y no esclarecidos

a los casos sobreseídos y archivados por los tribunales en el informe no se contabilizan otros sesenta y cinco asesinatos en manos de etarras que fueron amnistiados

por lo tanto ciento noventa y siete serían víctimas de eta diez del batallón vasco español diez corresponderían a los gal y en los tres restantes no está clara la autoría a estos casos habría que sumar otros veintinueve de grupos terroristas de extrema derecha de los que no hay datos

representarían el veintitrés coma dos por ciento del total de sus víctimas mortales en fin este informe dice algunas cosas más usted lo conoce tan bien como yo y en todo case se señala en este informe y se destaca

se han prestado a colaborar en el informe y el señor jonan fernández dijo también la semana pasada que este informe

avanzar en tres líneas de trabajo ofrecer un reconocimiento singular y personalizado a las familias de estas víctimas continuar con el trabajo de clarificar lo ocurrido y contribuir con la difusión de este texto al derecho a la justicia

por el terrorismo ya hemos pedido la comparecencia de los autores de este informe en este

cosas más concretas queremos más información en relación al trabajo realizado queremos saber con qué organismos asociaciones o instituciones públicas colaborado queremos saber si han pedido ayuda o colaboración por ejemplo a los autores del libro vidas rotas que es un extraordinario estudio sobre los asesinatos cometidos y los autores son florencio domínguez rogelio alonso y marcos garcía rey

de las diferencias existentes en relación al número de asesinados por eta ya digo que el gobierno de españa hablaba en su momento de ochocientos veintinueve

y el gobierno vasco habla ahora de ochocientos cuarenta y nueve

quisieron colaborar en la elaboración de este trabajo si quizás sea consecuencia directa del rechazo que provoca el señor jonan fernández

por qué no se incluye el asesinato de carlos díaz arcocha el día siete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco como uno de los asesinatos cometidos por eta pendientes de resolución y creo que este es un lugar común que comparten

todas las víctimas del terrorismo por qué en lo que se refiere al asesinato

el día treinta de julio de dos mil nueve se señala que es una causa instruida en francia o por qué se considera que

no es un asesinato pendiente también de resolución y aparece en ese informe con sentencia y como resuelto por qué las diferencias en relación

para considerar que un asesinato cometido por eta está digamos resuelto

por todo esto queremos preguntarle y evidentemente también queremos preguntarle por las acciones que va a llevar a cabo a partir de ahora el gobierno vasco para esclarecer
todos estos atentados terroristas no resueltos a día de hoy gracias eskerrik asko maneiro jauna

efectivamente señor maneiro el pasado viernes el gobierno vasco presentó el informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones

y dos mil catorce usted ha dicho bien que el gobierno encargó la elaboración de este estudio

a un equipo compuesto también por enara garro profesora de derecho penal y licenciada en criminología al señor josé antonio martín pallín magistrado emérito del tribunal supremo y al señor josé manuel rodríguez uribe exdirector general de apoyo a las víctimas del terrorismo del ministerio del interior

usted me interpela para conocer los propósitos del lehendakari en su caso una vez conocido el informe sobre atentados terroristas sin resolver yo

el equipo que ha elaborado este informe ha mostrado su disponibilidad para poder presentar el informe final a todos los grupos parlamentarios

realmente considero de interés que el equipo pueda comparecer ante los grupos parlamentarios

el saber con qué metodología de trabajo han operado

ya por la fiscalía la audiencia nacional la propia fundación de víctimas del terrorismo

en todo caso insisto que creo que es de interés ahora bien creo que el propio equipo de trabajo ha dicho que el informe es inacabado que hay que seguir dando pasos los propios autores han puesto de manifiesto que están abiertos a que el trabajo sea completado y que sea mejorado y que es un informe en un diálogo con la realidad con la realidad que han podido trabajar insisto que se ha realizado a pesar de la nula colaboración de algunas de las instituciones del estado que mejor podrían haber coadyuvado

más consensuados entre todos los informes que hasta ahora usted también ha citado y otros que podríamos citar no creo que

resida una animadversión ni un prejuicio con respecto a quien sea secretario general de paz y convivencia porque es tanto como decir que es una animadversión

o es para el propio equipo elaborador de este informe en todo caso

en las previsiones establecidas en el plan de paz y convivencia concretamente

y acciones derivadas responde además a una de las recomendaciones expresas del informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco mil novecientos sesenta dos mil trece presentado también en junio del pasado año y responde igualmente a una reivindicación de distintas asociaciones de víctimas beraz

argituta ikusi creo sinceramente que este informe

es un paso adelante en el deber de clarificación del pasado en relación con la vulneración del derecho a la vida y el derecho a la justicia de las víctimas y el resultado del informe aporta datos precisos para conocer cuántas familias de víctimas mortales de atentados perpetrados por organizaciones terroristas

ha dicho y también lo reitero al menos ciento noventa y siete familias de víctimas mortales provocadas por eta

se trata como usted también ha apuntado de un veintitrés por ciento de las víctimas provocadas por eta de ellas ciento cincuenta y cinco corresponden a las décadas de los setenta y los ochenta

que no han obtenido una sentencia esclarecedora del caso se trata en este caso del veintinueve por ciento de sus atentados y además no hay datos

y es bastante probable que muchos de ellos tampoco hayan obtenido una sentencia todos estos casos ocurrieron insisto en la década de los setenta y de los ochenta existen además otros tres casos de autoría desconocida o confusa que tampoco han obtenido una sentencia

dicho esto y le reitero la disposición del equipo de trabajo en cualquier caso el gobierno vasco quiere analizar con más detenimiento este informe en todo caso y usted ha mencionado también las primeras líneas de trabajo que ahora podemos avanzar como gobierno vasco son las que ha citado en boca

insisto también o reitero tres cuestiones reconocimiento clarificación y justicia y todo ello además cumpliendo lo que es la ley de víctimas del terrorismo

es ese marco en el que nos vamos a conducir como gobierno vasco reconocimiento ofreciendo un reconocimiento singular y personalizado a las familias de víctimas de asesinatos que no han encontrado una sentencia esclarecedora

a responder al derecho a la verdad de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y también

y compartiéndolo con las instituciones legislativas con las instituciones judiciales y con las instituciones ejecutivas también con las asociaciones y con los agentes sociales para instar y coadyuvar al cumplimiento del derecho a la justicia de las víctimas beraz maneiro jauna el informe tiene carencias

que con esas instituciones con las que no se haya podido trabajar se pueda trabajar en el futuro a ese trabajo compartido estamos abiertos

lehendakari yo le he realizado una serie de preguntas concretas a las que usted no ha sabido responder hemos pedido ya digo la comparecencia de los autores

porque creo que estas preguntas y sus posibles respuestas podrían poner de manifiesto lo que usted ha venido a plantear y a reconocer hoy que estamos ante un informe inacabado entonces la pregunta que yo quiere hacer al gobierno es por qué presenta un informa

por qué presenta el gobierno vasco un informe inacabado y efectivamente es un informe que contiene

podemos decir que son muchos más de los que aparecen en ese informe estaríamos hablando de

y aquí se habla de menos de doscientos con lo cual la pregunta es por qué el señor jonan fernández pregunta o presenta un informe incompleto

su trabajo mire hasta ahora había digamos un principio fundamental perfectamente asentado se considera que si no hay

ante un asesinato sin esclarecer esto era un principio fundamental que todas las víctimas del terrorismo y la sociedad en su conjunto admitía cuando no hay autor material

equivoca los términos y por eso es un informe con errores un informe

informe inacabado vamos a ver es imposible hacer una radiografía real y veraz del fenómeno de los asesinatos no resueltos si solo tildamos de sin resolver aquellos que están archivados o que han sido

pero no explica que dentro de esas sentencias hay una tipología y esto que le estoy diciendo es muy importante sentencias condenatorias para todos los colaboradores los autores materiales

sentencias condenatorias para todos los autores materiales sentencias condenatorias para informadores o para algún colaborador y esto no se tiene en cuenta

no significa que el crimen esté resuelto este es el error principal que comete el gobierno vasco las sentencias pueden ser absolutorias condenatorias también

o condenatorias para todos los autores materiales y condenatorias para autores materiales e intelectuales pero en todo caso el principio fundamental a tener en cuenta es si no se conoce el autor material del asesinato es un crimen que está pendiente de resolución con lo cual este informe está mal hecho no es que esté inacabado o incompleto es que contiene errores de bulto y esto es lo que nosotros queremos decirle y esto es ciertamente algo que nos preocupa mucho por eso digo que hay errores

sin esclarecer son muchos más de los que se señalan en ese informe estaríamos hablando según los trabajos realizados durante los últimos años de más de trescientos crímenes cometidos por eta pendientes de resolución

tiene que saberlo y evidentemente se lo recordaremos cuando puedan comparecer ante la comisión correspondiente porque aquí hay muchas cosas que corregir

de este grupo de trabajo que ha realizado este informe ya digo hay errores de bulto y en todo caso también me interesa saber qué es lo que piensa hacer el gobierno para ayudar a esclarecer estos crímenes cometidos por

eta y todos los crímenes cometidos sin esclarecer qué actuaciones piensa llevar a cabo en fin una vez que el informe efectivamente esté bien hecho gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor maneiro hacer demagogia con estos temas es fácil es fácil y creo que usted

o pleno de control tras pleno de control usted ha mezclado los autores del informe

al señor jonan fernández como si fuera un ente autónomo

cuando depende directamente del lehendakari cuando no es el que ha elaborado el informe cuando usted mismo ha reconocido que ha solicitado a la comparecencia

que los propios autores del informe en su presentación dijeron que han tenido dificultades para tener datos ofrecidos

y sin embargo usted viene aquí a hacer una intervención con una pretensión de meter el dedo en el ojo del lehendakari diciendo que el lehendakari no ha sabido responder cuando el lehendakari le dice

su disposición a aclararles cuales son las dificultades o las trabas con las que se han encontrado para elaborar ese informe que sí que efectivamente es inacabado

en función de que haya aportaciones suficientes para saber si es que los otros informes que hasta ahora se han publicado son correctos o no son correctos que también puede ser qué mejor prueba

señor maneiro mire yo le pido una reflexión porque enfrentamos un tema complejo y delicado no es tan fácil decir que un informe es el correcto y el otro informe por ser inacabado por todas estas circunstancias que seguro que se las explicarán como también el señor josé antonio martín pallín

o el señor josé manuel rodríguez uribes también le aclararán también lo que puedan ser

los casos pendientes de resolver o los casos que hayan sido sentenciados

cuál es la situación procesal y no a usted ni a mí

decir cómo hay que conceptuar los atentados y casualmente los atentados de eta estamos hablando también de todos los atentados señor maneiro insisto

y creo que es importante insistir y subrayar que es el eje

analizada la problemática de los asesinatos no resueltos porque son las víctimas y su derecho a la justicia y la verdad las que nos tienen que importar en esta cuestión

segundo criterio para el gobierno vasco el criterio del realismo

y la misma consideración a las víctimas exige realismo y no podemos crear falsas expectativas con posibles actuaciones del gobierno no debe obviarse sino reconocer que la complejidad de la tarea

y el tercer criterio la responsabilidad institucional nadie puede garantizar señor maneiro que todos los casos sean resueltos y serán resueltos pero debe asegurarse con todos los medios que la investigación judicial se desarrollará hasta el máximo posible y esta es también nuestra vocación

orainaldira ekartzen dugu errealitate hori este informe insisto creo que ayuda a configurar y comprometer el puzzle sobre nuestro pasado por muy

hoy es más fácil recordar y más difícil olvidar este informe

no han encontrado todavía una sentencia esclarecedora y además traemos esta realidad al presente para enfrentarla sin demagogia y con seriedad creo que este informe sirve para hacer pedagogía también para recordar y no olvidar

que acarreó el terrorismo creo que es una forma más de contribuir a los derechos de verdad justicia y reparación que corresponden a todas las víctimas eskerrik asko